landutakoak nuestro programa por lo tanto es desde luego abierto y flexible ahora bien reitero el compromiso del gobierno de cumplir este programa

a estos efectos nuestro plan de trabajo cumple con las tres condiciones de coherencia madurez y flexibilidad necesarias para lograr este objetivo a la hora de presentar

como sus señorías quieran definirlo el programa legislativo es acorde con los dos ejes

el crecimiento sostenible y el desarrollo humano de hecho podemos decir que forman un todo que define la estrategia de la presente legislatura respondemos así

compromisos con los que nos presentamos ante la sociedad vasca y que establecimos en un programa que definimos como participativo comprometido y realista

somos conscientes de que las iniciativas legislativas que hemos planteado requieren de un proceso de madurez que evaluamos en su primera fase en doce meses de trabajo y este en el que estamos es un primer tiempo el tiempo necesario para cumplir con los requisitos de análisis de las necesidades

evaluación de la afección y redacción de los contenidos de la futura ley o del proyecto de ley en cada caso la propuesta que realizamos es flexible nace abierta insisto el gobierno es muy consciente de la necesidad y de la conveniencia de tejer

por lo tanto este proceso abierto y flexible requiere tiempo y lo tendrá de la mano del gobierno vasco en su compromiso pero aun así

cada uno de los departamentos ha elaborado una memoria explicativa de cada proyecto de ley

esta memoria está guiando la actuación de los departamentos dado que en la misma se establecen con claridad los cuatro apartados básicos de cada proyecto en primer lugar el objetivo de la regulación propuesta

a una serie de demandas y necesidades sociales en segundo lugar la determinación de los sectores sociales que pueden verse afectados por la nueva regulación

la aplicación de la nueva ley y en cuarto lugar el calendario específico de presentación del proyecto de cada proyecto ante el consejo de gobierno y su posterior remisión

que ya hemos dado los primeros pasos en la elaboración de una memoria explicativa por parte de cada departamento en cada uno de los proyectos de ley mencionados en lo que es

aprobar buenas leyes por lo tanto requiere tiempo y buena técnica legislativa y esto supone reflexionar escuchar a todas las partes tomar decisiones razonables

sean claras precisas rigurosas inteligibles y respetuosas en segundo término el consejo de gobierno ha aprobado el programa legislativo

este programa responde además a las cinco prioridades presentadas en primer lugar la mejora de la regulación en el ámbito de los servicios esenciales a la ciudadanía como son

la educación la sanidad y el tercer sector de intervención social en segundo lugar los proyectos de ley orientados a la reactivación económica y la competitividad como son la ley de cooperativas la ley de cajas de ahorras el estatuto de mujeres agricultoras

o la ley vasca de empleo en tercer lugar las reformas legislativas para potenciar el crecimiento sostenible salvaguardando el medio ambiente

o de prevención de la contaminación del suelo en cuarto lugar la ley de administración pública que supone el compromiso firme en avanzar hacía una gestión eficaz ajustada y moderna de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía y en quinto lugar

una ley que viene a completar la regulación de la organización político administrativa de la comunidad y que delimita la arquitectura institucional las competencias relaciones entre las instituciones vascas estas mismas prioridades están recogidas en el programa con que nos presentamos hace poco más de un año ante la sociedad vasca

y que vamos a desarrollar en la presente legislatura nuestro compromiso social se centra como es

se asienta en los dos ejes del crecimiento sostenible y el desarrollo humano

como en la cohesión y el equilibrio social esta es la orientación que se recoge también en el programa legislativo que hoy presentamos este es el objetivo central de la regulación que plantean los proyectos de ley que estamos proponiendo y dicho que hemos trabajado o estamos trabajando en cada uno de los departamentos

durante estos diez primeros meses de legislatura tanto el gobierno como el parlamento hemos avanzado de forma muy significativa en el campo legislativo

por la iniciativa de los propios grupos parlamentarios cosa que no me duele en prendas en reconocerlo he comenzado por citar la aprobación del programa legislativo por el gobierno y la redacción de las respectivas memorias y quiero subrayar este trabajo realizado por los departamentos porque estas memorias preparadas

participación consenso y aprobación de las leyes estas memorias recogen además los objetivos y compromisos del programa con que nos presentamos ante la sociedad vasca y esta primera fase de trabajo interno culmina hoy con esta presentación del programa legislativo ante el parlamento esta es la primera ocasión

un programa legislativo lo subrayo porque es el mejor exponente del espíritu de colaboración y acuerdo con que desde el gobierno afrontamos esta legislatura

la producción legislativa ya sea por iniciativa del gobierno como también recogiendo la iniciativa de los grupos parlamentarios y en esta primera fase hemos hecho mucho más el gobierno presentó y se aprobó en esta cámara el proyecto de ley para abonar la paga extra a los empleados públicos correspondiente a las navidades del año pasado

ante esta cámara en un tiempo que todos ustedes conocen y en estos momentos el gobierno ha aprobado y puesto en marcha el procedimiento interno de ocho proyectosde ley

algunos de ellos se encuentran muy avanzados como es el caso de la actividad comercial la ley de puertos o la de prevención de la contaminación del suelo quiero subrayar que fruto de la iniciativa legislativa del parlamento en estos meses se han presentado en la cámara cinco nuevas proposiciones de ley por los diferentes grupos parlamentarios así mismo en estos primeros diez meses se han aprobado ya dos leyes

la iniciativa y la actividad legislativa tanto en lo que se refiere al trabajo interno del gobierno y a la presentación de algún proyecto como también a las iniciativas legislativas en el propio parlamento ha sido alta para los diez meses que llevamos a mí juicio junto a todo ello como saben sus señorías el gobierno aprobará dentro de lo que es

su producción legislativa aprobará el próximo martes el anteproyecto de ley de presupuesto para dos mil catorce que será remitido a esta cámara para su tramitación

los acuerdos políticos e institucionales alcanzados propician el clima necesario para contar en dos mil catorce con un presupuesto aprobado y en vigor

y me van a permitir profundizar en este proyecto de ley por su importancia y por el momento que estamos viviendo como primer proyecto de ley

periodo de sesiones presentará el propio gobierno el presupuesto para el próximo ejercicio debe encajar la necesidad de favorecer la reactivación económica y a la vez

la prioridad está en gestionar con rigor y mayor eficiencia garantizar los servicios públicos esenciales para la ciudadanía y construir el futuro de euskadi

diru sarrerak ere gehitu egingo direlako gure ahaleginik handiena alor horretara zabalduko da saben sus señorías que el primer principio de este gobierno es el rigor económico

la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica y financiera del gobierno y el deber de obrar con responsabilidad y rigor en estos momentos los presupuestos o el proyecto de presupuesto el proyecto de ley de presupuestos que presentemos a esta cámara

y pactados con el gobierno español vamos a ser estrictos también en la aplicación de los ingresos que fueron concertados en la pasada reunión

gracias al consenso alcanzado el gobierno vasco va a poder disponer de trescientos cuarenta y nueve millónes de euros más en el ejercicio próximo dos mil catorce solo por esta vía

son los servicios públicos esenciales para la ciudadanía su garantía pública y universal el proyecto de ley de presupuesto contemplará como una prioridad ampliar la dotación a sanidad educación y protección social son los primeros servicios destinatarios del incremento de recursos disponibles un segundo compromiso

y este compromiso viene acompañado por la elaboración del proyecto de ley de la administración pública vasca

se vea destinada de forma directa a los servicios públicos esenciales la reactivación económica y el empleo

y vamos a seguir aplicando el rigor este año dos mil trece el gobierno podemos decir que ha ahorrado doce millónes de euros de gasto corriente cada mes y el tercer objetivo

estamos en un momento de cambio de evolución y transformación en lo económico y social el plan de reactivación económica y empleo es central para el gobierno y la acción esencial del gobierno es apostar por la empresa la competitividad y los nuevos sectores la innovación y la internacionalización apostar por abrir oportunidades económicas

bermatu behar ditu como colofón a lo que es la presentación del programa legislativo

también para el ejercicio dos mil catorce reitero que la semana que viene aprobaremos por tanto el presupuesto que euskadi se puede permitir en estos momentos

un momento que va a seguir siendo duro pero que requiere de una acción presupuestaria clara que garantice los servicios públicos y que construya el futuro económico y social de euskadi el proyecto de ley de presupuestos de dos mil catorce se sumará a partir de la próxima semana por lo tanto

y cierro mi primera intervención volviendo otra vez a lo que es el programa legislativo diciendo que el programa legislativo presentado de la décimo legislatura establece los objetivos concreta las prioridades

la producción normativa del gobierno este programa muestra el compromiso firme en avanzar hacia una gestión más eficaz ajustada y moderna de los recursos públicos

recoge los compromisos que adoptamos ante la ciudadanía hace suyos los objetivos de crecimiento sostenible y desarrollo humano que representan el eje central

objetivo el gobierno vasco concibe este documento que hoy presentamos como un texto vivo y dotado por lo tanto

podrá irse actualizando adaptando y perfeccionando en la medida en que las necesidades sociales lo puedan exigir por eso la reiteración de que es un programa abierto

efectivamente el gobierno aprobó el pasado día veinticinco de junio el calendario legislativo de la actual legislatura contiene veintinueve proyectos

dos años hoy nos presenta el lehendakari este programa después de diez meses con una nula iniciativa legislativa por parte del gobierno vasco en concreto se plantea la remisión a este parlamento de trece proyectos legislativos durante el primer semestre de dos mil catorce seis proyectos legislativos durante el segundo semestre de dos mil catorce ocho proyectos legislativos durante el primer semestre de dos mil quince y

de dos mil quince hay en este listado de proyectos legislativos algunos que consideramos ciertamente importantes y otros que podemos decir que

y también hay determinados proyectos que plantean modificaciones de leyes que nosotros consideramos importantes pero cuyo contenido no va a colmar las aspiraciones obviamente lo iremos viendo en todo caso determinadas incógnitas siguen sin despejarse y se deberán despejar en el futuro

legislativo y de qué manera con quién o quiénes acordarán ustedes estas leyes y el contenido definitivo de estas leyes que al fin y al cabo es lo que interesa a los grupos de este parlamento y a los ciudadanos vaya por delante señor lehendakari que upyd se compromete a tener una aptitud constructiva en relación al debate

legislativos es decir que seremos críticos pero constructivos que seremos firmes en lo esencial y flexibles en lo accesorio

de nosotros mismos tanto a través de enmiendas como a través de nuestras propias ideas y argumentos obviamente tendremos tiempo de posicionarnos en relación

señor lehendakari les toca señalar y definir las prioridades políticas tejer complicidades tejer acuerdos y elegir

determinadas leyes importantes como por ejemplo por citar alguna la ley municipal

de los partidos políticos vascos durante las últimas décadas en relación a los proyectos legislativos que echamos de menos nosotros echamos de menos una ley de transparencia

de acceso a la información y la participación que veremos finalmente en qué queda en todo caso esta ley nos parece ciertamente importante obviamente hablaremos cuando llegue su contendido pero en todo caso consideramos fundamental aprobar una ley de transparencia o una ley

una serie de principios que nosotros consideramos fundamentales para garantizar la máxima transparencia y el derecho a la información de los ciudadanos vascos una ley que supere los límites planteados

aprobada es decir que vaya más allá de lo que va la ley nacional una ley que se rija por el principio democrático según el cual el derecho que los ciudadanos tienen de conocer los asuntos públicos no es una concesión de los poderes públicos sino efectivamente un derecho de la ciudadanía

es un derecho fundamental de toda persona una ley que deje claro y asegure que el derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas a todas las administraciones y a todas aquellas entidades privadas que reciban dinero público con independencia de la cuantía de dinero público que reciban

se aplica a toda la información elaborada recibida o en posesión de las entidades públicas sin importar cómo esté almacenada que siga un principio máximo que la información no se concede a los ciudadanos sino que la información es de los ciudadanos

el conocimiento y el uso del derecho a la información y que recoja sanciones también y que promueva el desarrollo de un portal de transparencia que incorpore información que ahora mismo no se encuentra en irekia

este portal de transparencia un registro de contratos un registro de adjudicatarios un registro de convenios de colaboración y un registro de

en definitiva que tenga claro que todas las personas tienen derecho a solicitar cualquier información a todas las administraciones e instituciones públicas sin tener que explicar para qué la quieren o qué uso darán a la misma y que tienen el derecho a recibir una respuesta

una ley de transparencia que reduzca las zonas de opacidad y las prácticas oscurantistas que favorecen la corrupción el despilfarro y la mala gestión

que recoja en todo caso los principios señalados más allá de que es cierto que ustedes incluyen una ley que tiene como objetivo mejorar la transparencia en todo caso veremos el contenido de ese proyecto legislativo además también echamos de menos que no se incluya en el calendario legislativo la reforma de la ley de territorios históricos obviamente nos dirá el lehendakari que ya está constituida una ponencia sobre la materia sin embargo

argumentario posible del lehendakari esta ponencia no se ha reunido en todo el año y la modificación de la ley de territorios históricos no puede esperar

que tenga como objetivo racionalizar el entramado institucional vasco clarificar la distribución de competencias entre el gobierno vasco las diputaciones y los ayuntamientos que suprima

sistema institucional pensamos que la ponencia sobre duplicidades solo va a posponer las medidas necesarias y que además durante la ponencia que se puso en marcha la legislatura anterior ya se dijo todo lo que se tenía que decir y que por lo tanto hay que pasar de las palabras a los hechos por eso nosotros consideramos que es fundamental que el gobierno plantee una modificación de la ley de territorios históricos que tenga esa serie de objetivos hay que pasar por lo tanto de la reflexión y la filosofía a los hechos nosotros llevamos desde el dos mil nueve pidiendo al gobierno que incluya en el calendario legislativo la modificación de la lth lo volvemos a hacerlo hoy

fundamental por lo tanto lth y ley de transparencia como tal en relación a las ausencias y una más que queremos señalar la ley de e i te be para modificar el procedimiento de elección del director general de e i te be y para modificar el procedimiento de elección de los miembros del consejo

con el objetivo de alcanzar la máxima profesionalidad objetividad independencia veracidad calidad e imparcialidad del ente público nosotros en ese sentido

el próximo jueves en este mismo parlamento en relación a proyectos legislativos planteados cuyo objeto nos parece claramente insuficiente destacamos la ley electoral donde prácticamente se plantean casi cuestiones técnicas nosotros defenderíamos la modificación de la ley electoral vasca para introducir

las listas abiertas la prohibición de compatibilizar varios cargos y alguna cuestión más como la obligatoriedad por parte de los partidos políticos de elegir por primarias

nosotros insistiremos en este asunto porque nos parece importante no hay que quedarse en meras cuestiones técnicas hay que modificar en nuestra opinión la ley electoral para alcanzar

cuyo proyecto dice el gobierno que presentará en los próximos meses

upyd señor lehendakari arrimará el hombro y dará lo mejor de sí mismo para tratar de alcanzar la mejor ley municipal y con ánimo constructivo porque efectivamente

una ley municipal para ordenar el reparto competencial de euskadi una ley municipal que

por las corporaciones locales que sitúe a los municipios en el lugar que les corresponde que reforme y modernice la estructura de nuestras administración local que garantice

de los municipios que facilite e impulse también la fusión de los municipios más pequeños y que facilite la presencia de los ayuntamientos en el consejo vasco de finanzas obviamente hay otros proyectos legislativos de gran importancia que incidirán

la sanidad la educación y en general el bienestar de los ciudadanos

insisto señor lehendakari nosotros vamos a tener y practicar un ánimo constructivo con todos estos proyectos legislativos que usted nos presenta hoy creo que en esto se debería centrar el gobierno vasco en general todos los gobiernos en hacer

corregir las obsoletas y modificar las que sean necesarias con el objetivo fundamental de mejorar la vida de los ciudadanos no en impulsar debates absurdos como el nuevo estatus político o la consulta ilegal señor lehendakari sino que el objetivo tiene que ser

corregir las obsoletas y modificar todas aquellas que sean necesarias en todo caso determinadas incógnitas siguen sin despejarse y se deberán despejar

si se cumplirá el calendario legislativo con quién o quienes acordarán ustedes estas leyes y el contenido definitivo de estas leyes en todo caso el gobierno y usted señor lehendakari deberá fomentar el diálogo

y buscar acuerdos y en relación al proyecto de presupuestos del que usted ha hablado también en la mañana de hoy

a partir de la próxima semana nosotros pediremos que sean unos presupuestos sin recortes sociales unos presupuestos que fortalezcan el estado del bienestar

digno y de calidad unos presupuestos en definitiva que sirvan a los ciudadanos vascos y que sirvan para salir de la crisis en todo caso insisto señor lehendakari upyd tiene ánimo constructivo

a través de enmiendas a través de los argumentos hacer que esos proyectos legislativos que hoy se plantean puedan finalmente convertirse

que sean útiles para el conjunto de los ciudadanos vascos gracias eskerrik asko

mesedez isiltasuna por favor

muchas gracias señora presidenta egun on guztioi señor lehendakari señores consejeros señorías

en este caso una vez más el calendario legislativo y es verdad que aunque en muchas ocasiones este

prácticamente desde la primera legislatura

incumplidos por los sucesivos gobiernos es cierto que el artículo octavo

habla de la necesidad de que el gobierno establezca un programa legislativo

de coordinar la iniciativa legislativa que al ejecutivo le corresponde

es verdad que la materia sobre la que hoy debatimos y que usted nos presenta ya nos la ha contado señor lehendakari

de mayo de este mismo año si atendemos también a los antecedentes y a sus antecesores en el cargo concluimos sin errar

como le decía en numerosas ocasiones una mera declaración de intenciones no poco importante pero una mera declaración

y como dijo cervantes en el quijote si me permiten la cita cada uno es hijo de sus hechos a nuestro juicio el doble lenguaje del partido nacionalista vasco cuando

al gobierno encuentra un acomodo claro cuando están gobernando incumplen lo que dicen que harían cuando gobiernen

presentaban una iniciativa en la que instaban al gobierno vasco a remitir a la cámara

el programa de gobierno que incluya los proyectos de ley y planes a aprobar durante la legislatura una vez en el gobierno dicho

consejos doy para mí no tengo comprenderá señor lehendakari que la

en las propuestas legislativas está más que comprometida lo que para usted es necesario presentar en dos meses pasan a ser más de diez cuando están en el gobierno y es convendrán conmigo una peculiar vara de medir y lo que por encima de otras consideraciones

iniciativa legislativa que usted nos anticipa en este debate sobre la que entraré a continuación lo que resulta verdaderamente preocupante de su gobierno señor lehendakari

en un momento histórico necesitado de muchas cosas pero necesitado fundamentalmente de liderazgo y determinación la situación económica

política por la que atravesamos necesita y demanda líderes necesita de claridad necesita despojarse de miedos

la constatación de que usted señor lehendakari está representando al menos en estos meses está representando exactamente lo contrario

diez meses después de su nombramiento cómo podemos valorar que sea hoy cuando debatimos algo tan gráfico y determinante sobre lo que su gobierno pretende cuando su gobierno lleva camino

señor lehendakari hoy no es un día en el que usted pueda estar satisfecho lamentablemente

nos deja un panorama difícilmente defendible y lo que es peor que no augura nada nuevo

su propuesta anticipa un fracaso palmario porque diez meses después de su investidura

están en disposición de cumplir los posterga hasta junio de dos mil catorce casi veinte meses después del inicio de la legislatura

de la legislatura es decir que este recién estrenado periodo de sesiones

con la salvedad del reintento de proyecto de presupuestos lo que a nuestro juicio

de los veintinueve proyectos contemplados trece se fían al primer semestre de dos mil catorce seis

y los diez restantes al dos mil quince pero es que

incluyen proyectos recurrentes en los sucesivos calendarios como la ya tan manida ley municipal para junio de dos mil catorce

en sus incumplimientos solemnemente anunciada y solemnemente frustrada en apenas dos meses desde su comparecencia sustancial

de este mismo año donde presentó su programa de gobierno cuando el veintiocho de junio se aprueba en consejo de gobierno el calendario con el que comparece

incumplimiento el estatuto del joven agricultor la ley vasca de educación la ley de víctimas de la violencia contra las mujeres permítame un recordatorio

los fueros de gipuzkoa editados en mil seiscientos tres

que las leyes han de ser pocas claras y breves para el buen gobierno que las leyes sean claras se refería

y que sean breves desde luego compromete al legislador y es cierto que aunque en nuestro ámbito y entorno hay una tendencia

o se legisla mejor debe de primar siempre lo cualitativo sobre lo cuantitativo en eso seguro que también estamos de acuerdo

necesarias pero en cualquier caso la decisión

debe de fundarse en la fortaleza de un gobierno no es su debilidad debe de sustentarse en la idoneidad

no su cantidad en la debilidad del gobierno la iniciativa legislativa y el suyo lamentablemente además de débil se está demostrando inane dice mucho de su gobierno señor lehendakari que mientras la ley vasca de empleo se proyecta

y remarquemos la fecha ley vasca de empleo con la que está cayendo junio de dos mil quince o la ley municipal

la prioridad legislativa del pnv se ha centrado en cosas como suprimir la celebración del estatuto de autonomía llama poderosamente la atención las prioridades que ustedes demuestran no dejade ser paradójico por tanto que hoy veinticuatro de octubre víspera de celebrar

que no ha necesitado para supresión de su celebración de aquello sobre lo que los vascos encontramos

el estatuto de autonomía cuya supresión digo como fiesta sea instrumentalizada a través de una proposición de ley de su grupo parlamentario cierto pero que no ha necesitado de ningún calendario

mire señor lehendakari en estos meses usted ha hablado más de independencia de nuevos marcos jurídicos sí sí

de nuevos marcos jurídicos de rupturas de consensos que de lo que pretende hacer con la responsabilidad y capacidad que tiene para gobernar euskadi

ha sido más noticia por anunciar en dos mil veinte dos mil quince no sabemos ya cuando será la ruptura de los marcos de convivencia que en decirnos cómo quiere legislar y cómo quiere gobernar euskadi y esta vez no nosotros creemos señor lehendakari que esta vez no

ni en dos mil veinte ni mañana la situación no está para bromas ni para más tensiones la situación no está para nuevos enfrentamientos y más brechas entre vascos

de que gobiernan en analógico cuando el mundo abre ventanas

anhelan un tiempo pasado que no volverá acéptenlo y el problema no es que ustedes se equivoquen en esa manera de entender el mundo y el gobierno el problema es que cuando se gobierna así los vascos y euskadi

retraso lehendakari se lo décimos una vez más diez meses después vivimos tiempos extraordinarios en los que necesitamos también políticas y políticos extraordinarios necesitamos altura de miras necesitamos liderazgo y los enjuagues políticos en virtud de los cuales un gobierno alcanzaba mayorías parlamentarias a golpe de parches

ya no son útiles y su problema no es que esté solo o en minoría su problema es que se niega a aceptar la realidad de una situación política y económica que demanda grandeza entendimiento y grandes acuerdos

lo que le impide soltar amarras como lehendakari mire nuestro ofrecimiento y nuestra propuesta es que lidere usted el entendimiento

no busque parches no busque parches busque soluciones

no se conforme con microacuerdos aunque estén muy de moda ambicione grandes pactos sea usted osado señor lehendakari se lo puede permitir

y acepte la inmensa fortuna de ser lehendakari de una euskadi tan diversa

para demostrar que acepta este ofrecimiento que le ha hecho el partido popular a través de arantza quiroga hace muy poco tiempo

donde ustedes van a poder demostrar si tienen esa altura de miras para gobernar euskadi desde el entendimiento

en la que nos ha tocado vivir y lo que nos ha tocado ejercer política de lo contrario los calendarios legislativos

en una pared y lamentablemente no estamos para eso muchas gracias eskerrik asko sémper jauna euskal talde sozialistaren ordezkaria den pastor jaunak dauka hitza

en lo que toca en el día de hoy que es el calendario legislativo

y a su gobierno por volver al saludable ejercicio del calendario legislativo un ejercicio de planificación y de transparencia que fue abandonado durante una década por el anterior tripartito nacionalista

que por cierto en esta primera parte de la legislatura ha sido prácticamente abandonada por su gobierno

ha sido a iniciativa de la oposición o de otras instituciones distintas a esta cámara nos presenta hoy un calendario

en el mes de mayo y que acabó aprobando en el mes de junio y que su consejo de gobierno aprobó hace casi cuatro meses por lo que es ya bastante conocido por esta cámara un calendario que en algunos aspectos se le está quedando ya viejo porque usted no previó por ejemplo revisar la lth a pesar que para esa fecha estaba ya acordada la constitución de una ponencia parlamentaria al respecto

tienen ustedes firmado con el grupo socialista un compromiso para que esa actualización esté aprobada antes del treinta y uno de diciembre del dos mil quince y dada su complejidad que se vaya pensando ya en el plazo que se necesita para que la tramitación esté finalizada antes de esa fecha como debiera actualizarlo también para la ley de educación

en el calendario legislativo y qué ocurre entonces con una ley que según palabras de la propia consejera iba a ser el remate final de un proceso de revisión de nuestro currículum educativo como antídoto para la ley wert por cierto un anuncio de un proyecto de ley

porque hay que reconocer que son ustedes originales primero aprueban los decretos

eso sí que es una innovación en todo caso se agradece la planificación

y precise ya de unas cuantas actualizaciones pero como le dijimos en su día

y en otras tampoco como el pnv en esto de las exigencias como ustedes mismos señalan en el acuerdo de gobierno este debe ser y lo es un instrumento dinámico que se debe ir acomodando en función de las necesidades o por circunstancias sobrevenidas criterio del que yo me felicito pero que supone una enmienda a la totalidad a los sucesivos discursos que su partido ha mantenido aquí en esta misma cámara la pasada legislatura y al final es dar la razón a lo que los socialistas explicamos

y que ante la sordera permanente del grupo nacionalista vasco en esta cámara se empeñaban en hablar de incumplimientos de inacción y de no sé cuantas lindezas más que no se correspondían con la realidad y no es ningún invento dese un paseo por las hemerotecas o por la web de este parlamento y se podrá comprobar

el lehendakari viene a explicar a esta cámara una propuesta de trabaja que efectivamente habrá que adaptar a la coyuntura a las nuevas necesidad pero también a los mandatos de esta cámara

de momento desde que decidieron dar este año dos mil trece por perdido para todo decisión materializada con una nonato proyecto presupuestario todo el peso

de la acción política y legislativa ha recaído aquí en este parlamento desde aquí desde el parlamento vasco ha habido que empujarles para que se movieran o para que tomarán medidas que interesan a los ciudadanos como las compensaciones por el repago sanitario o para buscar soluciones a los afectados por las preferentes

a un año vacío y hoy tenemos tres leyes aprobadas una es del gobierno

desde aquí desde nuestro grupo y en contra de su criterio nos hemos puesto a trabajar para dar un marco legal al problema de la vivienda

durante treinta años de autonomía desde aquí también desde el grupo socialista nos hemos puesto a trabajar para definir nuestro papel como políticos

y reconocemos las dificultades legislativas de un gobierno en su primer año cómo no nosotros sí les podemos conceder el margen

no voy a entrar en el detalle del calendario que proponen porque es su propuesta y nos corresponde atender a lo que nos remitan a la cámara y a aportar en todo caso lo que consideremos cada grupo político ya le adelanto que en lo que hace referencia al grupo socialista no vamos a provocar ni promover acción alguna de boicot a los debates

en otros tiempos le apuntaré tan solo que sí sería conveniente que en la próxima actualización que nosotros desearíamos que se hiciera a finales de este año

porque como ya se vio la pasada legislatura la situación económica o la disponibilidad presupuestaria condicionan seriamente la intención legislativa le añado como observación que veo en este calendario pocas prisas en alguna materia

del medio ambiente el proyecto de protección de medio ambiente está previsto para finales del dos mil quince y ese plazo con esa ley

le proponemos que lo adelante y lo haga bastante en el tiempo porque en este momento ya el gobierno de españa está adoptando una serie de decisiones legales medioambientales que nos parecen lesivas para los intereses del país vasco y las actualizaciones que ustedes plantean debiéramos realizarlas cuanto antes en todo aquello de nuestra competencia de paso le invito también a que recupere un texto muy trabajado en la pasada legislatura que estaba solo pendiente de la aprobación del dictamen tras consensuar las aportaciones de todos como es la ley del cambio climático

y que tiene nada más el último empujón para poderse tramitar en esta cámara y le pido también que en lo posible trabaje en los proyectos muy directamente con los sectores afectados y busquen complicidades previas y me detengo un instante en una de esas leyes nos consta que están trabajando con agentes de la economía social la reforma de la ley de cooperativas que pretende traer en el primer semestre del próximo año según su calendario visto lo ocurrido por desgracia en estos días

que refuerce un modelo que los socialistas defendemos como es el modelo cooperativo que nos parece además especialmente útil para que salgan adelante proyectos emprendedores

sitúe las cooperativas en lo que deben ser empresas de responsabilidad compartida y adecuadas a sus posibilidades reales eliminando aquellos aspectos de la legislación actual que trata de asimilarlos en la práctica a cualquier empresa mercantil anónima y no es ese el espíritu del movimiento cooperativo porque hemos comprobado por desgracia los efectos que no son buenos para las propias cooperativas para los socios para los empleados y para miles de ciudadanos vascos que tienen sus ahorros atrapados en ese bucle

y no de bloqueo y por supuesto decirle también que ese espíritu de colaboración no es un cheque en blanco ni mucho menos lo que no nos guste como llegue lo rechazaremos

aprobar las leyes por lo tanto tendrán que trabajarse los acuerdos necesarios para que las leyes puedan salir adelante en este parlamento y le recomiendo que los esfuerzos los realicen antes y que les resulten útiles a los ciudadanos

válido de actuaciones y no una especie de catálogo de frustraciones le reclamamos también que junto a la propuesta de leyes nos traiga cuanto antes un calendario de planes y actuaciones significativas porque no todo se puede regular por ley o se debe hacer

o estratégicas que se abordan por planes que deben ser sometidos también a la participación ciudadana y al consenso político lo que no se puede hacer es presentar mediáticamente planes

o no cuentan con el concurso de los agentes afectados y por ello

un acuerdo asegurado pues efectivamente se traen así han hecho ustedes con el plan de uso del euskera que al recuperar el trabajo del gobierno anterior sabían que no tendría obstáculos pero han eludido traer a esta cámara algún otro proyecto como los planes de empleo

le recomiendo celeridad en la medida de lo posible con la flexibilidad necesaria para solventar esa especie de inacción y de parón legislativo

de la cámara vasca para comprobar que propuestas legislativas del gobierno ha habido dos

y producción legislativa del resto once nueve de ellas de los grupos de las cuales cinco son del grupo socialista y una más junto al pnv y en cuanto al resto

la cuarta parte este último mes y si nos limitamos a las de impulso de la acción de gobierno además de dos plenos monográficos a principios de legislatura y otro hace un mes más de un centenar de asuntos sobre los que fijar posición o indicar al gobierno

que deben ir sus actuaciones este es el balance hasta la fecha un balance legislativo que corresponde prácticamente en exclusiva a este parlamento señor lehendakari no a su gobierno

que traigan propuestas que se impliquen en soluciones al menos como lo está haciendo este parlamento y en concreto el grupo socialista muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

que no tiene una ley de la vivienda zer egin pobretzearen aurka aipatu dudan bezalaxe gizarte

desde hace dos años hay condiciones objetivas mejores y yo diría

si las condiciones objetivas son mejores entonces tendremos que hablar de condiciones subjetivas da la impresión

ha apostado por reforzar el status quo ve la independencia como una utopía deseable pero inalcanzable

que no hay ganas y sobre todo que no hay interés que no hay interés

autonomía por juntarla con el resto de los territorios vascos para construir euskal herria se ha apostado por una autonomía aguantar la tormenta

perder el menor espacio posible mejorar en lo que se pueda y estar a la espera de tiempos mejores es decir jugar a chica

posible ganar en el mus jugando a chica a no ser a no ser

da la impresión de que aquí se vaya a plantear órdago de ningún tipo nos gustaría saber exactamente cuál es

qué es lo que van a responder a los militantes a los votantes a los afiliados del partido nacionalista vasco

a esa reivindicación criticamos al partido nacionalista vasco precisamente por esa inacción por esa inmovilidad simultáneamente les planteamos que si se mueven van a tener compañeros de camino eta neu

ekintzak o hechos denbora bukatzen ari zait baina decía al principio el secreto

no me ha entendido y no tenía la traducción es algo tan sencillo como que evidentemente el parlamento está para legislar para controlar decía en euskera que las sesiones de control son la muestra evidente de la marcha del gobierno

la marcha de la oposición y hagan ustedes un repaso de las sesiones de control y verán a qué me refiero y

y cuando iñigo urkullu lehendakari y su gobierno se encuentran con una situación de bloqueo

porque estos acuerdos que han sido posibles hace un mes podían haber sido posible hace ocho y no lo fueron por qué porque había una estrategia compartida de decir al gobierno no de decirle no entonces

evidentemente el gobierno sigue gobernando porque las decisiones hechos reduciendo los altos cargos ajustar nuestro gasto al límite del déficit planes de empleo con las dotaciones de doscientos cuarenta millónes sesenta y cinco iniciativas más con el objetivo de crear diez mil empleos el trabajo de consenso con las instituciones

los planes de reactivación económica redimensionamiento del sector público emprendimiento etcétera para eso

necesitado de la aprobación de leyes es acción de gobierno

que hará que con unas cuentas ordenadas que es lo que necesitaba este país con el mantenimiento de los servicios públicos básicos podamos proyectar ese futuro también a compartir

se brinda desde esa coherencia y desde esa flexibilidad para compartir con el máximo grupos parlamentarios los conflictos necesarios para que esas leyes salgan adelante

bien en el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios comenzando por el señor maneiro

valoración y al mismo tiempo que una valoración ha planteado en dos o tres ocasiones

en relación a lo que es el programa legislativo presentado en la sesión de esta mañana y en las incógnitas usted subrayaba

legislativo subrayaba también con quién queremos sacar adelante

y también el contenido de los mismos proyectos de ley hombre señor maneiro me permitirá usted que a priori no le pueda despejar estas incógnitas a priori no le puedo despejar estas incógnitas recojo

y las recojo desde esta disposición que tenemos como gobierno a trabajarlo

y por lo tanto agradezco lo que es su disposición constructiva que también

con usted para debatir trabajar mejorar lo que puedan ser nuestras ideas en cada uno de los proyectos de ley

de reivindicar que la ley de transparencia que usted desearía fuera más allá de la estatal lo cual teniendo en cuenta la estatal pues tampoco deja mucho resquicio mucho margen de maniobra en todo caso reconoce usted

pueda estar incorporada en la ley de administración pública que nosotros planteamos en ese programa legislativo en ese índice de posibles proyectos de ley

ha hecho referencia también a la reforma de la lth a la ley municipal en este sentido como ha habido también intervenciones de otros grupos parlamentarios me detendré un momento más en concreto en relación a la lth

el hecho de que como gobierno presentemos un proyecto de ley de lth al mismo tiempo reconoce que existe una ponencia creada una ponencia creada para debatir sobre lo que es la reforma de la lth el hecho de que no se haya reunido como usted ha denunciado

no le imputara al gobierno vasco la responsabilidad de que la ponencia no se haya reunido pero existe una ponencia para hablar y debatir de la reforma de la lth ha hecho referencia también a lo que han sido opiniones o consideraciones con respecto a la posible reforma de la lth que se trabajaron en la legislatura pasada sí

contradictorias o contrarias o enfrentadas cuando menos lo cual exige que

reforma de la lth existe una ponencia también todo eso se trabaje en aras al mayor consenso posible la última cuestión que ha hecho ha sido o por lo menos que yo he recogido

ha hecho sobre la ley de e i te be o la necesidad de una ley de e i te be quiero recordarle que la dirección general de e i te be

ha reivindicado o ha reclamado y por último se ha dedicado a decir qué es lo que ha de hacer el gobierno

otros debates como el estatus curiosamente en sentido contrario a lo que también otro grupo parlamentario

yo recojo lo que es su disposición constructiva recojo no solamente en cada una de las iniciativas que usted ha subrayado como importantes sea la ley municipal como sea también la ley electoral a la que usted ha hecho referencia con sus consideraciones

y esa disposición constructiva la aplico para todo lo que pueda ser el trabajo que como gobierno tengamos que desarrollar

algo que usted mismo reconoce que hemos presentado en mayo y luego sin embargo lo utiliza para criticar que vengamos ahora diez meses después cuando ha reconocido que ya lo hemos presentado en mayo quedémonos con algo si lo hemos presentado en mayo yo plantee la iniciativa de presentar yo personalmente este programa legislativo

si estamos en la fecha en la que estamos tampoco será responsabilidad del lehendakari o del gobierno vasco el que después de junio que hicimos la petición de comparecencia estemos hoy aquí

ha hecho una comparativa con anteriores legislaturas hablando de los antecedentes entendiendo que puede haber una declaración de intenciones y ha hecho referencia también a

y también la referencia sobre lo que es el incumplimiento

como usted ha dicho y ha empezado por hacer una relación también de incumplimiento sobre la ley de transparencia

que usted ha dicho y que considera que es necesario creo que se refleja enel índice de proyectos de ley planteo en este programa en cuanto a no entrar en una competición de cuántos proyectos de ley quiere presentar este gobierno sino que los proyectos de ley que presentemos como programa legislativo y siendo que además es un programa legislativo abierto y flexible sea un programa legislativo de proyecto de ley que son a nuestro juicio

se ha dedicado también a la crítica a la debilidad del gobierno a la inane ha hecho referencia también a la ley de empleo y también

primero llevamos treinta y cuatro años en esta comunidad autónoma sin una ley de empleo treinta y cuatro años y somos el primer gobierno que trae un proyecto de ley o tiene en su programa legislativo la intención

treinta y cuatro años y hemos pasado de todo en esta comunidad autónoma en treinta y cuatro años

no necesariamente una ley de empleo es la que genera empleo tampoco en estas circunstancias que tenemos que abordar

tema no quiero entrar porque además no es una cuestión del gobierno como usted ha reconocido usted ha tenido una primera

de la cámara ha habido una decisión de la cámara a una iniciativa planteada en la propia cámara por los propios grupos parlamentarios o diversos grupos parlamentarios de la cámara

luego ya otra vez con las independencias y las rupturas de marcos como también anteriormente el señor

y ha exigido liderazgo o gobernar desde el entendimiento esto es lo que he dicho señor sémper

de andadura de este gobierno a buscar los acuerdos a entablar las conversaciones necesarias desde el diálogo con todos los grupos parlamentarios

que nacimos en minoría y estamos en minoría sí pese a acuerdos

y eso hace y exige que tengamos que buscar la vía del entendimiento la vía del acuerdo pero no en mi caso solo por necesidad que también es una necesidad

como manifesté en lo que fue el discurso el día del debate de investidura

sémper fue presentado en tiempo como usted mismo ha reconocido en tiempo y forma en el primer semestre de este año fue presentado usted me lo ha reconocido

no solamente el programa legislativo también el programa de gobierno el programa de gobierno lo presentamos también en el plazo de cien días y no voy a entrar en comparativas

y lo comparto comparto con usted estas prioridades y a la ley municipal también me he referido y me referiré también en orden a que también ha sido una cuestión como he dicho antes planteada por otros grupos parlamentarios pero siendo usted el que hace una apelación al gobierno sobre lo que son las prioridades en orden a valorar las prioridades que para usted desde la oposición son una apelación al gobierno en este caso se las podría haber aplicado también en la legislatura pasada

usted daba mayoría absoluta al gobierno en la legislatura pasada para poder promover estas iniciativas en la legislatura pasada que ahora reivindica para este gobierno vasco

y termino haciendo referencia con la ley de educación este es un tema que sí quiero también subrayar en relación a lo que han dicho otro grupo parlamentario a mí me gusta que en este tema

lo que sea la producción legislativa que hagamos en esta legislatura sea por impulso del gobierno o sea por iniciativa de los grupos parlamentarios además de haber nacido del consenso sea que esa producción legislativa

una legislación duradera y no sometida a cambios constantes

ha hecho un agradecimiento por la planificación a pesar de que luego ya ha entrado en la improvisación en el calendario ya superado que ustedes consideran en algunos de los

en respuesta a los grupos anteriores sobre la ley de educación insisto en que este es un tema que ustedes conocen que para mí es muy sensible también abordo esta reflexión desde la necesidad de profundizar en el pacto educativo existente

entendemos que hay un consenso suficiente para plantear un proyecto de ley yo no tengo ningún problema pero siempre en esta materia basado en lo que es el pacto educativo en eso contarán siempre con este gobierno con este lehendakari con su consejera y con este gobierno en su conjunto

del grupo nacionalistas vascos del grupo euzko abertzaleak no solamente han sido gestores del partido socialista quienes durante doce años han gestionado lo que es el ámbito de vivienda también ha habido gestores del ámbito de vivienda y en otros partidos políticos que hoy se sientan en la coalición de eh bildu

reivindica que es necesario precisar la incidencia económica en los proyectos de ley yo lo he reflejado también en mi primera intervención cuáles son las condiciones que se exigen para lo que es la presentación de cada proyecto de ley y efectivamente en un momento como estamos viviendo

en los proyectos de ley tal y como usted plantea denuncia pocas prisas en alguna materia y en concreto medioambiente

invita a recoger algunas de las cuestiones que ustedes plantearon en un programa legislativo en un calendario legislativo en la legislatura pasada

en relación a esta cuestión que no me provoca ninguna dificultad

las circunstancias que hoy estamos viviendo en todo caso ha mostrado disposición

la voluntad de que imprimamos celeridad ante lo que es una acusación de inacción

yo me he referido también durante estos diez meses a catorce planes estratégicos que hemos planteado desde el gobierno vasco y que

tenemos los catorce planes estratégicos bien identificados en cuanto a lo que es el calendario la incidencia económica también prueba de ello es que usted ha

y saben ustedes como grupos parlamentarios el tiempo que nos hemos dado como gobierno para

tiempo en el que estamos y tiempo que gestionaremos desde la voluntad también

y de integración para enriquecer el borrador de plan que nosotros

tal y como he dicho en mi primera intervención en cuanto a lo que es la educación me he referido también en la respuesta anterior

de ahí la necesidad de un pacto educativo profundizado y que si es necesario podamos plantear un proyecto de ley consensuado previamente de manera suficiente que perdure en el tiempo y tomo nota de su propuesta de avanzar en la ley de medioambiente y en la ley de cooperativas no

el consenso necesario para que las leyes salgan lo mejor posible

y no por el hecho de tener que contar con mayorías sino que sean mayorías amplias y que sean sólidas para lo que puedan ser legislaturas posteriores

el programa presentado es una propuesta abierta es una propuesta flexible

el gobierno insisto no quiere correr el riesgo de proponer leyes que duren lo que dura su mandato nuestro objetivo es plantear leyes fruto del mayor acuerdo posible la relación de iniciativas legislativas planteadas son una clara muestra de la voluntad de acuerdo de gobierno son leyes a nuestro juicio importantes

por parte de todas las distintas sensibilidades políticas sociales y territoriales del país mantengo este espíritu de acuerdo porque la producción legislativa es

ante las incógnitas que se me han planteado esta legislatura tiene que tener su desarrollo y será al culminar esta legislatura cuando podremos valorar

tomando en consideración el número de leyes aprobadas así como su importancia y el periodo de vigencia no es tanto el número de leyes

un tiempo bien invertido el que hasta ahora hemos invertido con el trabajo que estamos haciendo elaborando las memorias

estoy convencido de que el trabajo que estamos realizando nos va a permitir cumplir los compromisos adquiridos en el ámbito de la intervención legislativa e incluso superarlos nos encontramos en la primera fase sí nos encontramos en los doce primeros meses en esa fase preliminar

solo demando que a este gobierno se le juzgue por sus hechos

planteadas no voy a entrar en comparativas con lo que han sido legislaturas anteriores porque creo que habría posibilidad de decir

de la producción legislativa y el cómo de aquella producción legislativa

o en un calendario legislativo dejaron sin ser planteados cuántos de ellos fueron planteados y sin embargo no vieron la luz al final bueno no voy a entrar en esta cuestión simplemente quiero resaltar

en mi intervención inicial que la producción legislativa no está basada hasta ahora solo en lo que es la iniciativa del gobierno sino también lo que es la iniciativa de los grupos parlamentarios

para el abono de la paga extra he citado el proyecto de ley de presupuesto nonato sí el proyecto nonato de dos mil trece la aprobación del programa legislativo por el gobierno dando respuesta al compromiso también adquirido en este parlamento los días

he citado la elaboración de las memorias de las veintinueve propuestas de ley así como la puesta en marcha del procedimiento en ocho proyectos he citado la aprobación de dos leyes y además

otras cinco proposiciones de ley alguna de ellas planteadas conjuntamente con el grupo nacionalistas vascos que es el que

me eligió como lehendakari y hoy comparezco en esta presentación del programa legislativo siendo que es un hecho que no se habido producido nunca con anterioridad he dado cuenta de nuestros compromisos

y por lo tanto la actividad legislativa hasta la fecha considero que ha sido alta no solo por lo que pueda ser

y a mi modo de ver el trabajo realizado puede garantizar el cumplimiento de los compromisos planteados mucho de ello también basado en lo que es la disposición que

en las intervenciones de los grupos parlamentarios y que invita a pensar que tenemos que trabajar en ese esfuerzo de consenso dos cuestiones que sí me parecen importantes y que se han destacado por diversos grupos parlamentarios la ley municipal y la lth

en esta segunda intervención sobre estas dos cuestiones nuestro compromiso es presentar el proyecto de ley municipal el primer semestre del próximo año ese es

se ha trabajado mucho para poder sacar adelante ya un proyecto de ley municipal

y mi confianza es que en esta legislatura logremos el consenso suficiente definitivo ya para hacer realidad esta ley y cerrar con ello la arquitectura institucional vasca y este es mi compromiso primer semestre del año que viene

reitero también que efectivamente no está incluida en nuestro calendario porque la iniciativa corresponde como creo a lo que es el trabajo de los grupos parlamentarios existiendo una ponencia ya creada a tal efecto en este parlamento

conocen y vuelvo a reiterar nuestra disposición a analizar la modificación de esta ley

el gobierno vasco lo asumiremos como no puede ser de otra manera algunas de las cuestiones que se han planteado sobre todo por el grupo socialistas vascos en cuanto a recoger

y alguna denuncia que ha hecho con respecto a lo que ha sido o no la iniciativa del gobierno en sí la iniciativa de los grupos parlamentarios

no hemos considerado pertinente como gobierno el recoger en el programa legislativo iniciativas o proyectos que estaban contemplados en su programa en la legislatura pasada como son el de la movilidad sostenible o el del transporte por cable sin embargo en la ley de mitigación y adaptación al cambio climático en relación a lo que también

le diré que está integrada en lo que es la nueva ley de protección del medioambiente en cuanto a la ley de ordenación del paisaje esta cuestión será regulada por decreto y que la ley de juventud fue rechazada por este parlamento y eso nos lleva también a la consideración sobre la pertinencia

suficientemente consensuado previamente no solamente con los grupos parlamentarios sino también con los sectores afectados parte de los contenidos en todo caso de esos proyectos de ley se incorporarán señor pastor a proyectos que se encuentran en elaboración

lo reitero otras materias que creo que no requieren rango de ley y que sin embargo puedan ser desarrolladas mediante decreto en cualquier caso tengo la

el planteamiento en la legislatura pasada insisto que nuestra propuesta es abierta es flexible por lo que podemos incorporar o podremos incorporar

y cierro también efectivamente con esa disposición a lo que pueda ser el proyecto de ley de cooperativas en esa apelación que usted ha hecho y que también he recogido en

el caso fagor electrodomésticos ha puesto de manifiesto que compartimos algunas ideas básicas como es la idea de

en estos momentos críticos entorno a la empresa la necesidad de preservar la actividad y el empleo que tenemos a través de una apuesta concertada pública y privada la necesidad de ganar

pero en relación a lo que es el modelo cooperativo y el marco de lo que pueda ser una ley cooperativa evidentemente

compartida y en este sentido recojo también lo que ha sido la apelación en sentido positivo a lo que tiene que ser dar respuesta a una
buena ley recogiendo también la experiencia de lo que está sucediendo en estos momentos besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

sí gracias presidenta señor lehendakari a mí me da la sensación de que usted ha venido aquí con la intención

al presentar el calendario legislativo de gobierno y sin embargo en fin no voy a decir que haya sido vapuleado por los grupos de la oposición

todos ellos puesto en evidencia de alguna manera porque todos tenemos conciencia clara y sabemos qué es lo que ha ocurrido durante estos diez meses de gobierno y puesto que ya sabemos lo que ha ocurrido

cuando usted ha presentado este calendario legislativo todos los grupos le hemos recordado la inacción política de este gobierno o al menos la inacción legislativa y en todo caso la lentitud legislativa de este gobierno que además se pone de manifiesto también en la presentación de este calendario legislativo ya digo todo ello por la inacción palmaria durante estos diez meses

en fin haber caminado solo durante todo este tiempo decía usted en esta segunda intervención que quieren que se les juzgue

yo creo que los grupos parlamentarios están para juzgar al gobierno

es decir esa es la labor de los grupos de la oposición juzgar al gobierno durante toda la legislatura no solo

que durante estos diez meses prácticamente no han hecho nada y se han caracterizado por la inacción política y en todo caso la inacción legislativa es un hecho que ustedes llevan recordándonos diez meses que aprobaron en diciembre la ley para el abono de la paga extra de los funcionarios llevan diez meses recordándonos ese único proyecto de ley en fin escaso balance diez meses después presentan un calendario legislativo que empezará a ponerse en marcha a partir del próximo año por tanto se cumplirá año y medio sin que el gobierno vasco

y seguramente nos iremos hasta finales del próximo año sin que ningún proyecto legislativo del gobierno vasco se haya convertido en ley hecho que demuestra ya digo

de este gobierno es decir ninguno de los proyectos que el propio gobierno vasco considera necesarios

durante los primeros dos años de legislatura o en todo caso nunca antes del primer año y medio es decir ninguno de los proyectos que ustedes mismos consideran necesarios aprobar

los suyos propios ninguno de los veintinueve proyectos legislativos va a ser aprobado

dos años esto evidencia una lentitud en todo caso lo viendo y en todo caso la principal incógnita se mantiene que creo que está en la mente de todos los portavoces y todos los grupos de la oposición cómo vasco inactivo hasta la fecha en iniciativas legislativas va a ser capaz de sacar adelante estos veintinueve proyectos legislativos durante los próximos tres años

y con quién evidentemente y por qué ninguno de estos proyectos ha sido presentado en este tiempo por qué ninguno de estos proyectos legislativos ha sido presentado durante los primeros diez meses y por qué ninguno de ellos se va a presentar hasta dos mil catorce estas son

durante todo este tiempo y usted me insistirá en que han trabajado a fondo ocho proyectos legislativos de estos veintinueve pero en todo caso la realidad es que año y medio después

año y medio después ningún proyecto legislativo habrá llegado a este parlamento año y medio después ustedes sonríen les parece que es el ritmo habitual de cualquier gobierno a nosotros nos parece que ustedes son ciertamente

en fin yo le he planteado algunas cuestiones ley de transparencia efectivamente veremos en qué queda la lth en lo que siempre insistimos nos dice que existe una ponencia el problema no es solo que exista una ponencia que no se reúne

una sola vez durante todo este tiempo el problema no es que la ponencia no se reúne sino que nosotros consideramos que esta ponencia ya no es necesaria porque ya hubo una ponencia durante la pasada legislatura y ya los grupos saben qué es lo que tienen que decir en relación a este asunto y para nosotros lo urgente es que este gobierno traiga su proyecto de modificación de la lth y nos pongamos ya todos a modificar esa ley

la ley electoral me gustaría saber qué opina sobre la posibilidad de instaurar la circunscripción electoral única introducir las listas abiertas o las primarias obligatorias para todos los partidos políticos yo le he planteado ya

modificación legal entramos ya por lo tanto en el contenido y me gustaría conocer su opinión y también le he citado la ley de e i te be ya sé que al director general

modificar la forma de elección del director general de e i te be y queremos también modificar la forma de elección de los miembros del consejo de administración

actual forma de elección no garantiza la independencia la objetividad y la imparcialidad y queríamos preguntarle qué le parecería a usted modificar estas formas de elegir tanto al director general
como a los miembros de consejo de administración maneiro jauna amaitzen

lo propondremos un asunto más venía a decir el señor egibar

o cosa parecida porque lo ha planteado aquí como un logro de este gobierno yo quería preguntar si efectivamente el gobierno ya

se ha redimensionado porque el señor egibar lo ha planteado aquí como que el gobierno ya lo ha hecho ya ha redimensionado

ya el problema es que este parlamento le instó al gobierno vasco a presentar el plan de redimensionamiento antes del treinta de junio de dos mil trece

no se ha presentado y pedimos la comparecencia del consejero en junio y llegará en noviembre es decir todo va a paso de tortuga en este gobierno esto es a lo que yo me quiero referir y por lo tanto le pido que se pongan las pilas que comiencen a legislar

y que atiendan las necesidades de los ciudadanos gracias presidenta

gracias señora presidenta con la intención absolutamente sincera de ser breve porque creo que este debate ya no da más de sí pero voy a comenzar explicando alguna cosa que antes no ha quedado suficientemente clara

quizás seguro que el problema lo tengo yo y para mí los plazos son diferentes de lo que son para ustedes y

las elecciones autonómicas se celebraron si no recuerdo mal en el mes de octubre del año dos mil doce este mes hace un año lo digo porque vamos a contextualizar un poco la situación de lo que es la calle

que se manejan en la calle y de los tiempos que se manejan en la política una año

las elecciones autonómicas y un año después un gobierno

de un gobierno nos presenta un programa legislativo esto nos debería hacer al menos reflexionar sobre los tiempos de la política y en este caso

tiene la inmensa tarea y responsabilidad de gobernar y de hacerlo además

sí extraordinariamente compleja que requiere de un extraordinario esfuerzo y que requiere de una iniciativa política también

y la crítica que yo le hago señor lehendakari que le hacemos el lamento que compartimos si prefiere con usted es que un año después de haberse celebrado unas elecciones autonómicas no es un triunfo no es presentable políticamente presentar

con los inmensos retos que tenemos por delante y que usted ha asumido liderar su resolución y no lo está haciendo bien en tiempo ni en forma porque es verdad el dos de mayo de este mismo año

en esta comparecencia de hoy daré respuesta conjunta a dos peticiones por un lado presentaré el programa legislativo del gobierno para

y hoy nos viene a presentar lo mismo lo que le quería decir es que perdemos el tiempo en una especie de espiral de bucle del que no salimos nos vienen a presentar cosas

el gobierno decidió gobernar desde el primer día hombre faltaría más todavía le vamos a tener que dar las gracias que el gobierno decidiera gobernar desde el primer día

ya es que no hay lugar a la discrepancia porque es que no hay materia de discrepancia es que estamos hablando de inacción que usted ponga en valor señor egibar que este gobierno decidió gobernar sobre eso sí que podríamos discutir que el portavoz del partido nacionalista vasco diga en esta tribuna que

llama poderosamente la atención que lo ponga como un valor de este gobierno porque además la responsabilidad es de la oposición

de la oposición que bloqueaba y dice como respuesta si algo ha tenido este gobierno es capacidad de análisis hombre

es que entre la capacidad de análisis y la decisión de que va a gobernar ya se han ganado el sueldo y no

excepcionales y si no interpretan eso ustedes cometerán errores como los que ya están empezando a cometer y por eso le decía antes señor lehendakari

más pereza que a mí no le da a usted pero lo que

eufemismos y por eso le decía vamos a ver usted es miembro de un partido político

como objetivo político fundamental la independencia de euskadi

esto le debería de encantar a usted señor egibar no sé por qué le molesta su objetivo fundamental es la independencia digo porque vamos a intentar aclararnos por que es bueno también con lo cual

está encaminada entre otras cosas a la consecución de la independencia de euskadi con lo cual si usted quiere un nuevo marco

y lo que quiero decirle es que eso a

y su partido faltaría más entorpece perjudica

entorpece la acción política de un lehendakari

al país porque esos objetivos además de estar descontextualizados en un mundo como le decía muy abierto

nos pone en una gestión analógica y creo que a ustedes les despista pero además políticamente

y entorpece aún más su gestión porque juegan en un terreno compartido en un terreno

y eso además de toda la incapacidad de gestión que están demostrando perjudica como le decía también a euskadi porque perjudica también la acción

no estamos para bromas no estamos para perder el tiempo no estamos

para la acción el intentar resolver los problemas objetivos que tiene euskadi

una ley de empleo como no tiene ley municipal como tiene muchas carencias y muchas necesidades de gestión que abordar ahí es la cuestión

antes de romper antes de buscar nuevos marcos antes de buscar otros escenarios qué hacen ustedes con las herramientas
de las que disponemos en euskadi para gobernarnos mejor amaitzen sémper

a nuestro juicio y para esa clave usted tiene el ofrecimiento del partido popular de colaboración para utilizar las herramientas de las que disponemos de las que nos otorga nuestro ordenamiento jurídico para mejorar la calidad de los vascos que es para lo que estamos aquí

bloqueo bloqueo es la palabra bloqueo es la palabra que el señor egibar ha repetido en este parlamento como si fuera un mantra

y explicarlo absolutamente todo bloqueo

por qué el gobierno estaba desorientado por el bloqueo por qué no se traían leyes a este parlamento por el bloqueo y aquí nos desliza el pnv nunca tiene responsabilidades sobre lo que está pasando la culpa es de una especie de conspiración mundial del resto de los partidos políticos para jorobar

el problema no es el bloqueo el problema fue una decisión equivocada de ustedes de lanzarse a gobernar en minoría porque tomaron esa decisión desde el minuto uno que se conoció el resultado de las elecciones autonómicas y se equivocaron y se cayeron del guindo de la equivocación el día que tuvieron que retirar los presupuestos y entonces se acabó el bloqueo

acabaron por interiorizar que necesariamente tenían que buscar consensos más amplios

que le daba el partido nacionalista vasco por lo tanto no es un problema del bloqueo es decir no es un problema de los demás

ustedes tomaron una decisión lanzarse en minoría con veintisiete parlamentario a gobernar

con nadie no digo con nosotros con nadie con ningún otro grupo político de la cámara y eso provocó lo que provocó un gobierno que durante más de seis meses ha estado noqueado y que empezó a salir del marasmo el día que tuvo que retirar los presupuestos

que cambió el tiempo histórico de esta última legislatura bloqueo sabe usted lo qué fue el que hicieron ustedes para que no se aprobara la ley municipal en la anterior legislatura

promovido por cualquiera no por responsables políticos de su partido en las diputaciones bloqueo

la ley de vivienda eso sí fue bloqueo intencionado consciente y evidente también eso sí fue

un tanto extrañas algunas precisiones que le quería hacer al lehendakari

usted nos dice no yo me aparto de esta polémica es cosa de ustedes los grupos políticos planteen vale perfecto le recuerdo que no hace mucho tiempo

que no querían recogerlo aprobado y trajinado en este parlamento durante muchos meses porque era responsabilidad del gobierno poner en marcha el proyecto de ley municipal y por qué con el de ley municipal es el gobierno el que tiene que tomar la iniciativa

algo tendrá que decir el gobierno a mí me gustaría conocer cuál es el criterio del gobierno vasco sea o no sea del pnv cuál es respecto a la arquitectura institucional de este país y hasta dónde se pretende llegar en esta actualización o reforma de la lph

hay temas que están retrasados es verdad la ley de vivienda lleva retraso como lo lleva la ley municipal de más de treinta años de treinta y cuatro en concreto de los que treinta ha habido lehendakaris del partido nacionalista vasco luego alguna responsabilidad tendrán ustedes en el retraso de estas leyes

legislativo por parte de los sucesivos lehendakaris nacionalistas para promover la ley de vivienda o el grupo nacionalista vasco en esta cámara ha presentado alguna iniciativa ni con la ley municipal ni con la ley de vivienda ninguno cuándo se puso en marcha el proyecto de ley municipal en la anterior legislatura y no consiguió llegar a tiempo porque ya se ocuparon ustedes de que no llegara

y con la ley de vivienda pasó tres cuartos de lo mismo después de un intensísimo proceso participativo que ustedes despreciaron

y llega por iniciativa de este grupo no de ustedes ni del gobierno al que ustedes dan apoyo

que desde el punto de vista político han tenido los nacionalistas los sucesivos gobiernos nacionalistas en determinadas materias que son importantes para este país y en cualquier caso me sigo reafirmando y sigo haciendo un ejercicio de colaboración

y de entender que hay trabajo para trabajar conjuntamente pero por favor señor lehendakari trabájense los acuerdos con tiempo suficiente y recojan

pero sí le quería hacer una precisión muy concreta con el tema de la ley de educación que anunció la consejera y que no está en el calendario legislativo usted me dice

que quiere que se fragüe un gran consenso en torno a un pacto educativo le voy a poner una advertencia encima de la mesa el pacto educativo más sustancioso

en torno a ese pacto es donde queremos cosechar y poner en marcha el nuevo pacto educativo eskerrik asko

decía maneiro yo la verdad es que las referencias a la lth que una y otra vez usted hace

a veces me extraña porque precisamente la lth que configura

los territorios bueno que hace esa distribución competencial entre las instituciones

es lo que hace que usted esté en esta cámara porque si lleváramos

desarrolláramos mínimamente su tesis y habláramos de censo único y de territorio único

asumamos la contradicción que lleva cada cual por lo menos dígalo

en base a las resoluciones que usted propone y el ejercicio

el señor sémper que se repite el mismo pensamiento por activa y por pasiva y perifrástica pues no tiene desde luego mayor recorrido

lo que tiene que hacer usted es situarse en todo caso en la posición de cameron

una propuesta mayoritaria de definición o de decantación posicionamiento sobre la independencia será el partido popular quien habilite esa posibilidad

es lo que tiene que decir se habla de bloqueos

que cometimos el error en origen por no haber conformado una mayoría de gobierno lo intentamos también con ustedes les preguntamos

contemplan ustedes alguna posibilidad de colaboración de acuerdo con el pnv

ahí estuvo el problema ustedes no contemplaban otra posibilidad que la coalición de gobierno no importaba tanto el programa era estar juntos entonces

la tesis que formulan ustedes y urizar la semana pasada todavía

que hemos cometido un fraude porque dijimos que íbamos a gobernar en solitario y estamos gobernando ya con los socialistas y el partido popular

tesis antítesis síntesis el pnv

amaitzen joan egibar jauna seiscientos quince iniciativas veintinueve leyes catorce planes se ha hablado del plan

con sus dieciocho iniciativas también en resumidas cuentas políticamente también este gobierno ha tenido que abordar una serie de prioridades

ha marcado prioridades garantiza servicios públicos y la protección social programas de reactivación económica y de creación de empleo que van a necesitar del concurso de todos también de las institucionales

esas son las prioridades un gobierno que hace eso primero demuestra tener programa

y líneas de acción y una estrategia que se propone compartir

fuera de la realidad sino todo lo contrario pegado a la realidad y a las necesidades de este país beraz burua duenak